nos gustaría pero es que no tenemos competencias porque las tenemos tenemos las competencias para crear este consejo y si queremos mucho más también que podemos crear la propia ley audiovisual esto no es una erosión silenciosa perdóneme esto es una dejación

de visión como país es una falta de seriedad total una irresponsabilidad el gobierno se tapa los ojos para no ver pero el monstruo sigue ahí

egun on mahaiburu andrea egun on guztioi al momento en que vivimos se le llama sociedad de la información sociedad de la comunicación

en octubre según datos los individuos de más de dieciocho años de edad consumieron un promedio de doscientos noventa minutos de contenidos de televisión al día

lo que son casi cinco horas de contenido diario al graduarse un bachiller un chaval

de estas treinta y dos minutos diarios solo treinta y dos minutos diarios

junto a todo este contenido recibimos una media de un impacto publicitario cada diez segundos lo que

de los cuales noventa son recibidos por la televisión que son

con estos datos quería mostrar de una forma visual la importancia que la televisión tiene en nuestras vidas y mostrar la constante exposición a los medios

por eso con un mercado audiovisual tan amplio y ante tal ingente cantidad de horas de televisión

que vinculen a los actores y cuyo cumplimiento se les pueda exigir paradójicamente en el país vasco no se ha regulado en esta dirección

el problema viene cuando los procesos de autorregulación de las propias cadenas son insuficientes y es necesario la intervención de un tercero que establezca unas reglas y las haga cumplir pero quién determina que los procesos de autorregulación son suficientes o insuficientes la propia cadena pues no hay nadie más que les juzgue que ellos mismos a sí mismos ahí es donde debería entrar la figura de la autoridad reguladora cuyos fines serán los de garantizar el respeto la defensa y el pluralismo y la protección de todos los usuarios

los de los menores de edad y las minorías por eso nuestro grupo la legislatura pasada ya

y en aquel momento nos hacíamos y en este momento también nos hacemos eco de la directiva de los servicios de comunicación audiovisual

y en qué sentido pues en el sentido de considerar que los servicios audiovisuales son tanto de carácter cultural como de tipo económico

así como para la educación y la cultura se justifica que se apliquen estas normas específicas vemos necesario llevar a cabo

del respeto a los derechos libertades y valores recogidos en el estatuto de autonomía especialmente en relación a la protección de la juventud y la infancia el consejo de audiovisual de euskadi

del servicio público de comunicación con especial énfasis en la dimensión de servicio público como garantía del derecho a la información y a la cultura

el pluralismo la inclusión de la perspectiva de género la veracidad informativa

la protección de los derechos fundamentales la promoción de una sociedad más inclusiva

refiere a la participación ciudadana así como la prevención y eliminación de cualquier tipo de discriminación

jugar un papel destacado en la promoción del cine vasco y en la distribución de las ayudas públicas para la producción audiovisual este organismo se encargaría además de vigilar

con autoridad y con capacidad sancionadora y también supervisaría la concesión de ayudas públicas a los medios

de garantizar la pluralidad y la equidad distributiva también sería encargada de elegir quién dirigiría etb y quién formaría parte del consejo de administración todas estas y muchas funciones más son las que tienen asignados los diferentes consejos audiovisuales de europa desde inglaterra francia alemania grecia portugal países del este países nórdicos de hecho en el dos mil ocho

para la creación de este tipo de órganos reguladores con el objetivo de asegurar la independencia de los medios de comunicación en toda europa y permitía hacerlo tanto a nivel estatal como a nivel autonómico sin embargo ni españa ni euskadi tiene este órgano de control

y en lugar de poner remedio y crearlo con los estándares de calidad ya conocidos

contrario a su creación por qué dice el informe que hay un órgano que se encarga de regular lo que ya propone

cosa que no es del todo cierta dice el informe en el caso de e i te be al tratarse de un medio público existen tres foros de seguimiento y control

pero lo cierto es que ninguno de estos organismos tiene las funciones de un consejo regulador y mucho menos su independencia en la independencia de sus miembros o sus facultades ejecutivas

en el mejor de los casos pues la ley de e i te be se ha quedado ya muy vieja y para hacer frente a una nueva realidad audiovisual en el año dos mil veintiuno

en un consenso en un contexto social y cultural pero hace ya cuarenta años y que el gobierno vasco y los partidos que sustentan al gobierno

reformar esta ley también nos llama mucho la atención y a las pruebas de la legislatura pasada nos remitimos una ley la ley de e i te be que tampoco garantiza la igualdad entre hombres y mujeres y en cuyo consejo de administración no tiene ninguna facultad sancionadora ni ejecutiva también se hace mención en el informe desfavorable del gobierno a la existencia de una comisión de seguimiento del contrato programa pero este tampoco es un órgano que sirva para abordar lo que se propone en un consejo audiovisual se limita

a ver si cumple las bases de unos indicadores indicadores que han sido puestos en cuestión hasta por la propia actual dirección de e i te be cita a su vez

que curiosamente comparte funciones con la dirección de gabinete del consejero esta dirección es la encargada de los trámites para el servicio de comunicación audiovisual y la solicitud en materia de medios de comunicación social seguimos viendo falta de neutralidad que se le pide a los órganos reguladores

del servicio sí hacen referencia al observatorio europeo audiovisual a lo europeo sí pero a la creación de un autonómico no mejor sería tener uno aquí

creemos que es mejor y más eficaz unificar la dispersión de estos órganos de estas comisiones y de estos consejos en un marco de un solo órgano más eficaz y dotado de verdaderas capacidades de control regulación y sanción en consecuencia para garantizar la protección de los derechos se debe contemplar la creación de un consejo vasco de lo audiovisual como órgano responsable de su vigilancia y

este órgano actuará como un órgano de control externo a e i te be y del resto de medios de comunicación social que operan en la comunidad autónoma

si creemos en la independencia de este consejo y para no repetir los errores en cuanto a nombramientos políticos su composición debería dejarse en manos del parlamento vasco con un sistema de listas amplias de candidaturas que fueran votadas por los grupos permitiendo

la autoridad que se necesita es una autoridad neutra las autoridades administrativas independientes en el sector audiovisual deben actuar de forma

forma esta que no puede cumplir la administración pues la administración puede ser objetiva

pues tiene unas directrices de gobierno estas cuestiones y muchas otras podrían haber sido debatidas y enmendadas por los grupos de esta casa en el caso de que el voto hubiera sido favorable y la toma en consideración de la ley presentada por eh bildu

una u otra manera casi todos los grupos que están presentes en esta cámara

sí han estado a favor de la creación en algún momento de un ente de estas características

para mí solo puede ser una causa política pero desde el gobierno y desde los grupos parlamentarios que sustentan al gobierno han decidido dar por zanjado el debate hoy

útil en la sociedad de la información en la sociedad de la comunicación en la que estamos en la sociedad de los audiovisuales y con casi cinco horas de televisión al día

el dinero de todos es decir aumentar el gasto del estado a costa del esfuerzo fiscal de los ciudadanos en aras de crear nuevas agencias de colocación para amigos

o por su reiterado interés en lucrarse con el dinero de los contribuyentes o quizás ambas dicho esto tampoco sorprende ya que los intentos de la izquierda radical por controlar los medios de comunicación y censurar la información y la libertad de expresión

único obligatorio utilizando para ello todos los instrumentos de los que dispone la administración pública y la confluencia de estas dos tendencias es lo que viene a proponernos hoy el grupo bildu la creación del consejo vasco audiovisual un chiringuito carísimo que aumenta el gasto del gobierno vasco y el cual

en nuevas duplicidades estaría destinado exclusivamente a controlar el contenido de lo que se emita desde las diferentes entidades de comunicación de carácter público o privado dicho de otro modo un organismo que censura y además una censura que pueda ser hasta propia de regímenes comunistas cabe recordarles a sus señorías que la constitución española establece en su artículo veinte entre otros

mediante la palabra el escrito o cualquier otro medio de reproducción así como el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión así mismo establece que estos derechos no pueden restringirse mediante ningún tipo de censura previa

y jamás en ningún caso por un ente cuyos miembros han sido nombrados por los partidos políticos

sean elegidos tres quintas partes por el parlamento suponemos que para garantizar la independencia y objetividad de estos miembros verdad por tanto

a lo propuesto por bildu deben ser únicamente los juzgados y los tribunales de justicia los que determinen si una información es manifiestamente falsa calumniosa o injuriosa y en su caso la sanción o la pena a imponer por si esto no fuera suficiente el propuesto consejo vasco audiovisual tendría otros fines adicionales al de la censura el impulso del euskera con posibles acuerdos con navarra y la zona vascofrancesa para garantizar la diversidad lingüística es decir

a través de la administración pública dicho de otro modo otro intento del separatismo por enfrentar a los españoles a través de la politización del euskera con cargo al dinero público

y hayan rechazado la creación de un chiringuito más con el consiguiente gasto público que ello supone que ya tenemos bastante por cierto aprovechamos esta intervención para recordarles que la e i te be nos sale a todos los vascos la friolera de ciento sesenta y uno millónes de euros

y es una televisión que no trabaja con los principios éticos del periodismo verdad y precisión independencia imparcialidad humanidad y responsabilidad por el contrario es un ente público sectario y al servicio del independentismo por lo que sí que consideramos que debe tratarse más el pluralismo político y la objetividad algo que tienen pendiente en este ente

un gasto más sin ningún servicio al ciudadano es curioso que además se quiera instalar en determinadas comunidades cuando ni tan siquiera está instalado a nivel estatal

señorías se ha sometido a votación

al llamado consejo vasco audiovisual nosotros hemos votado en contra por razones de forma y de fondo en primer lugar por razones de forma mire forma y técnica legislativa lo cierto es que esta proposición de ley que se nos ha sometido a consideración en primer lugar

consejo vasco audiovisual en el título consejo vasco de medios audiovisuales en el artículo segundo

en segundo lugar hay unas contradicciones entre los artículos relativas a la aprobación de las rpt de la relación de los puestos de trabajo que yo creo que son impropias para la toma en consideración ya de partida de una ley o de una proposición de ley hay conflictos competenciales que se derivarían de la convivencia y que no están ni resueltos ni apuntados la forma de resolución con el regulador nacional con la cnmc

régimen sancionador que yo creo que es lo que está en la base de la propuesta en el fondo del grupo proponente el régimen sancionador es un régimen que no pasa un filtro mínimo de constitucionalidad por vamos ni siquiera un filtro mínimo de

no respeta los principios ni de legalidad ni de tipicidad no se sabe qué

en fin yo creo que desde un punto de vista digamos de forma pues lo cierto es que el proyecto es muy deficiente desde el punto de vista de los temas de fondo

parecían dos proyectos distintos por una parte el grupo proponente lo ha circunscrito a una serie de cuestiones que más bien parecería

audiovisual que eso sería una cuestión que se podría discutir lo que pasa es que la forma en la que ha sido propuesta pues entendemos que no tiene una sustancia suficiente como para pasar al siguiente punto es decir todos podemos cometer errores en la redacción de una propuesta y el primero

yo creo que sobrepasa los límites básicos no en cuanto a los temas de fondo miren los temas de fondo también hacen referencia a una serie de cuestiones

que no hay forma de reconducirlos se habla de

en fin de nuevo sale navarra la obsesión con navarra se habla aquí de otra vez la construcción de euskal herria la construcción nacional etcétera en fin cuestión de la estructura y la composición del consejo me ha llamado mucho la atención

sí que garantiza la independencia de los miembros en fin el presidente tiene que saber euskera se dice respecto al presidente del consejo vasco audiovisual esto es claramente inconstitucional por otra parte hombre ya faltaba por ahí que fuera también nacionalista en un momento determinado en fin

es una propuesta que tiene una técnica legislativa muy deficiente el régimen sancionador no es constitucional y yo creo que la propuesta en sí misma no es seria esta propuesta

a los medios domiciliados en el país vasco que dependerán

construye o crea un organismo que es verdad que va a tener un coste también muy importante sin acabar de definir tampoco sus funciones

de los espectadores y de los operadores y por tanto yo entiendo que no es posible darle el voto favorable a la toma en consideración además cuando cuenta con unas consideraciones tremendamente críticas por parte del gobierno y estas señorías estas son las razones por las cuales hemos votado
en contra de la toma en consideración muchas gracias eskerrik asko

gracias presidenta buenos días vicelehendakari consejeros señorías egun on guztioi espero que después de cómo hemos interpretado esta canción la audiencia nos absuelva

pues acabamos de votar la toma en consideración de esa proposición de ley que nos traía bildu en la que nos propone la creación del consejo audiovisual vasco

ante un debate limitado acotado parcial porque si hay un debate importante que es el que los socialistas hemos ido

desde hace mucho tiempo es el de nuestro servicio público audiovisual público

de redefinir cuál es el servicio público que queremos redefinir sus recursos sus contenidos que vayan dirigidas a una audiencia activa y también cómo lo estructuramos y lo adaptamos a las demandas y necesidades

que se refuerce su carácter de servicio público necesitamos es obvio una e i te be objetiva competitiva eficiente transparente que atienda a la realidad sociolingüística impulsando la normalización del uso del euskera y respete los principios de igualdad pluralismo político religioso y cultural y así lo hemos consignado en el acuerdo de gobierno para esta legislatura en el que nos alineamos para culminar el proceso de modernización que iniciamos hace varias legislaturas porque para los socialistas insisto

autogobierno y en ese empeño seguimos señora

plantea eh bildu pues no nos ha convencido efectivamente

muy interesante incluso antes de que eh bildu estuviera en este parlamento y pudiera participar en debates como este este debate es una vuelta de noria más a esa tendencia de plantear cuestiones parciales limitadas

y esta no la consideramos en este momento insisto en este momento ni necesaria ni prioritaria ni oportuna ni proporcional y además no nos parece que no está correctamente formulada ni desde el punto de vista de técnica legislativa ni tampoco desde el punto de vista jurídico

porque además señorías las cuestiones planteadas en esta propuesta están encauzadas y gestionadas por otros órganos y foros que existen y funcionan adecuadamente

de las que podemos disponer cumplen con todas y cada uno de los objetivos de la propuesta que por cierto son como más de treinta en orden a las cuestiones que pueda hacer muchas de las cuales

en el caso de e i te be existen tres foros de seguimiento y control el consejo de administración la comisión de control de este parlamento que por cierto tiene una actividad bastante

si le parece poco lo que recoge ese contrato programa es la encomienda de servicio público que se le exige a nuestro servicio público audiovisual

de medios audiovisuales tanto públicos como privados tenemos el servicio de medios de comunicación al que ha hecho usted mención que gestiona la tramitación y adjudicación de licencias de la radio y televisión todos los procedimientos sancionadores una de las pautas estrella y el registro de prestadores de comunicación audiovisual

que efectivamente se ocupa del asesoramiento y control para una comunicación y publicidad igualitaria

que intervienen en todo lo relacionado con la prevención y erradicación del racismo y la xenofobia en los medios de comunicación además del ararteko

en fin múltiples observatorios que tenemos que también hacen su función en este sentido y finalmente he de señalarle señora

comunicación audiovisual que va a incorporar y transponer la directiva

relativa a la prestación de servicios de comunicación audiovisual que va a fijar un nuevo marco básico

adaptado a la nueva y dinámica realidad en el sector audiovisual

y también por qué no nuestra propia ley

en euskadi porque como decía almudena grandes

el todo es la suma de las partes es mucho mejor que hagamos las cosas bien que terminemos de hacer lo que hemos venido a hacer y luego ya hablaremos de otras aventuras que a nuestro juicio son innecesarios muchas gracias

eta nik uste dut hainbat galdera plazaratu behar ditugula la primera de las preguntas que tenemos que plantear es es lícito es legítimo realizar un seguimiento constante y continuo al contenido de los medios de comunicación privados

poder dictar resoluciones de carácter vinculante o desarrollar incluso potestad sancionadora con respecto a sus contenidos pues es un debate complicado

la segunda pregunta es hay foros actualmente hay medios actualmente que nos permiten con respecto a esos objetivos que entendemos que sí que son imprescindibles

para controlar la igualdad de género en los medios de comunicación la comisión begira adscrita a emakunde hay foros también para el otorgamiento de licencias está el servicio de medios de comunicación social y también existen foros para la no discriminación de personas migrantes existen

hay masa crítica suficiente de medios privados que radican en euskadi que justifiquen la creación de este consejo

pues a la hora de juzgar la proporción tenemos que atenernos al coste

cuánto cuesta la factura y para analizarlo podemos acudir al caso que conocemos al caso de cataluña que tiene setenta y cuatro personas empleadas un presupuesto de cinco coma cinco millónes de euros y que en los momentos de mayor bonanza alcanza incluso los diez millónes de euros

un presupuesto muy importante y que hay que analizarlo con detenimiento y la labor del gobierno de este parlamento de las instituciones es administrar con eficiencia los recursos

un ejercicio y es que imaginen que hoy en vez de estar debatiendo

debatiendo un proyecto de ley imaginen que el gobierno propusiera hoy la creación de un consejo cuyos miembros fueran elegidos por este parlamento a propuesta de los grupos entre cuyas labores estuviera el seguimiento el control la fiscalización de los contenidos de los medios de comunicación

y que además contará con un presupuesto vamos a decir importante qué tendríamos que oír hoy hoy estaríamos oyendo que el gobierno quiere crear un chiringuito y que además quiere crear un órgano de censura para controlar a los medios de comunicación

pero la realidad es que el gobierno no ha aprobado ese proyecto de ley

porque no lo ha considerado necesario y nosotros en esto también pensamos igual que el gobierno y es por eso por lo que hemos votado en contra y aprovechando que me quedan unos segundos sí que me gustaría hacer una última reflexión y es que entendemos que hay que ser prudentes

la forma que tenemos de consumir contenido audiovisual hoy nada tiene que ver con la forma que teníamos ayer pero es que todo parece indicar que tampoco tiene nada que ver con la forma que vamos a tener mañana si en un momento entendemos que es necesaria una regulación la creación de un consejo que regule lo audiovisual tiene que ser en un momento en el que el sector esté estable

de continuidad es por todo esto por lo que hemos votado en contra besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko díez jauna gai zerrendako bigarren puntua mozioa

superior o si se prefiere jerga de piratería que creo que se ajusta más al caso se pretende dar patente de corso sobre el territorio a lakua en concreto a arantxa tapia hoy presente que oportunamente

en su macro cartera por eso creo que acierta el movimiento popular cuando habla de la ley tapia a partir de la aprobación de la ley si se aprueba tapia propone el gobierno dispone y los ayuntamientos se la comen eso sí

algunas que ahora sí podrán decir que no pueden hacer nada para parar un proyecto indeseado un proyecto nocivo o impopular o contrario

o todo ello a la vez yo no quería esto pero claro lakua lo impone y se suma se suma leixuri se suma a las líneas de alta tensión que os afectan tanto en labastida como en gatika se suma

se suma todo y remata la capacidad de los municipios

zertara datorren eta zer suposatuko duen esto básicamente es doctrina del shock

lo explicó perfectamente consiste en aprovechar una situación turbulenta para imponer unas medidas un programa político impopular utilizando una situación

alegando necesidades urgentes y por procedimientos de urgencia

de betoño hace poco hablaba de la urgente necesidad de imponerse a los ayuntamientos

es decir que no atienden al interés general imponerse digo ante el riesgo de colapso del sistema de tratamiento de residuos

ha insistido en la prisa hay mucha prisa mucha prisa

y prisa para qué yo creo que para entender lo que está pasando

en ese momento se derrumba el vertedero de zaldibar ante la indolencia del gobierno vasco presuntamente por unos empresarios imprudentes entre las muchas incapacidades que se destapan en zaldibar

un sistema organizado y de tratamiento de residuos industriales se le echa implícitamente la culpa al partido socialista y el pnv literalmente le quita la cartera le quita la cartera de medio ambiente se la da a tapia

pero claro después de ver cómo funciona el sistema en zaldibar quién quiere plantas de tratamiento de residuos en su municipio pues evidentemente nadie en pleno confinamiento primer intento un intento de impulsar una planta en azkoitia pero claro el municipio

salta la alarma hay presión se echa atrás hay otro intento en lezama también gobernado por el pnv

con vertedero de cola pero el municipio alega incompatibilidad urbanística para rechazarlo konpondu daiteke

es compatible con el planeamiento urbano si se aprueba la ley

y que el plan general se adapte al proyecto que eso es lo que trae eso es lo que comporta la declaración de los proyectos de interés público superior que el urbanismo se pliegue a los proyectos más el proyecto fantasma de corrugados tampoco era compatible con el planeamiento de azpeitia aprobado por unanimidad

y ahí está varado habrá más casos habrá más casos

territorial para que ponernos límite porque nos estáis diciendo

pero tampoco queréis limitar el efecto de la nueva disposición habláis de que solo se van a aprobar proyectos de interés social medioambiental pero qué es el interés social medioambiental dónde está escrito en ningún sitio interés social

va a ser lo que le parezca a arantxa tapia y ya hemos visto lo que sois capaces de hacer pasar por proyectos medioambientales y mejoras medioambientales

muy medioambiental y mucho medioambiental la incineradora complejo medioambiental subvencionar coches de diesel

aerogeneradores por todas partes medioambiental sin duda alguna porque en los mundos de

todo es mejora medioambiental es decir los proyectos de interés público superior de interés social medioambiental son la llave que abre la caja de pandora y si no al tiempo pero no es solo el qué porque es importante explicar cómo se está haciendo esto cuál ha sido el proceso porque tiene mucha miga la ocasión para dar este golpe a la autonomía municipal

pero también para imponerse a toda la planificación territorial y sus condicionantes ha sido

escrita y no culminada por el partido socialista en la anterior legislatura en esta legislatura arantxa tapia la presenta tal y como estaba redactada pero sin que el resto lo supiéramos

mientras tanto los informes y las comparecencias que fueron repetitivas porque el texto era el mismo el análisis del texto de la ley se hizo sobre el texto antiguo

otras intenciones ocultas en ese momento en junio el pnv con el partido socialista de comparsita presenta más de cien enmiendas y entre ellas

extensísima que ocupa nueve páginas en el dictamen de ponencia que podría ser una ley en sí misma

creando los ya tristemente famosos proyectos de interés público superior de la nada

a través de una enmienda a través diría del abuso de la técnica de la enmienda parcial se pretende crear una realidad jurídica nueva algo

ejercer lo que es nuestro propio oficio es decir el análisis de lo que se pretende legislar

así que no es solo cuestión de que tengan mayoría es que para sacar esto adelante incluso con mayoría tenían otras herramientas posibles como la proposición de ley

de un mínimo de garantías es decir entre las opciones que tenían han escogido la peor la menos garantista el caso es que al hacerlo así por la puerta de atrás de las enmiendas se ha impedido que esto pase por la comisión jurídica asesora ha impedido que el parlamento haya podido dar

el gobierno que ha sido quien le ha redactado al grupo

los ayuntamientos no han podido activar los mecanismos de defensa de sus competencias se ha impedido que actúe el consejo de gobiernos locales de euskadi vulnerándose

meridianamente claro que las disposiciones de carácter general como esta que afecten específicamente a competencias propias de los municipios como los urbanísticos serán objeto de informe previo preceptivo preceptivo por la comisión de gobiernos locales de euskadi no hay un solo informe sobre las repercusiones de los pip no hay un solo informe

no hay un solo informe sobre la seguridad jurídica de este cambio el único filtro que ha pasado este dislate es la mesa del parlamento y por cierto

qué análisis hicieron de esto y claro nos estamos rebelando ante este atropello ante este abuso en toda regla y los ayuntamientos también se están rebelando y cada vez son más incluso entre sus filas

y por eso hay tanta prisa incluso desde sectores del gobierno ha habido un intento

para que se metiera esto sin modificar la ley de ordenación del territorio pero claro no era posible había prisa

ustedes pues están forzando plazos adelantando comisiones mesas del parlamento hoy

y cuando se corre mucho pues se cometen errores y se quieren tapar con apaños

errores las reuniones de la ponencia fueron el cinco y el veintidós de noviembre y sin embargo está firmada el veintidós de octubre

esta última versión que salía de la ponencia el lunes y se envió a la mesa tiene dos disposiciones adicionales sextas en distintas partes del documento y lo que es peor hay un momento en el que directamente se pasa a la mentira a la mentira

manda el lunes a la tarde a todo correr después de que la comisión aprobara el dictamen de ponencia un oficio a la mesa del parlamento

que envía el resultado de la ponencia y de las enmiendas reservadas por los grupos parlamentarios eso está ese es el oficio y le estoy leyendo literal

la reserva de enmiendas para qué para que el martes a la mañana la mesa calificara

mucha prisa claro les pillamos y lo paramos de poco ha servido porque la mesa de hoy pues a todo correr pues ha puesto

pero a mí si me pillan en una mentira así de gorda o estoy buscando un agujero o estoy buscando la puerta a

con lo cual tendríamos otro problema porque entendemos que los letrados están para velar por el reglamento y no para forzarlo tienen demasiada prisa

saben que están generando malestar y saben que quieren cambiar las reglas del juego por la puerta de atrás y esto va a tener consecuencias profundas en este país laburbilduz

buenos días gracias presidenta pues miren lo que

es la enmienda que propusieron los grupos partido nacionalista y partido socialista

la modificación propuesta permitiría acordar la suspensión del planeamiento territorial mediante la declaración de proyectos de interés público superior

a propuesta del departamento que dirige la señora tapia la declaración de proyectos de interés público superior tal y como está propuesta implicaría que cualquier proyecto con supuestas mejoras sociales medioambientales tendría una jerarquía absoluta sobre los instrumentos de ordenación territorial actuales como los planes generales urbanísticos pgu ptp planes territoriales sectoriales dot y planes territoriales parciales

de ley de administración ambiental se sometió sin esa modificación sin ese concepto a la consideración de la comisión de gobiernos locales

que son los órganos encargados de informar sobre el proyecto de ley que se iba a debatir en este parlamento y eudel

que pudieran vulnerar la autonomía municipal esta modificación introducida vía enmienda en el trámite parlamentario

de ley a pesar de no existir un procedimiento que obligue a pasar de nuevo por la comisión de gobiernos locales entendemos que en una adecuada colaboración entre instituciones se debe abrir un diálogo desde el gobierno con eudel para escuchar la opinión

sobre el asunto un asunto de tanta importancia y de tanto calado antes de votar

y hasta aquí el relato objetivo de los hechos

aprobado por unanimidad por fuerzas políticas que en otros municipios en municipios por ejemplo como el que a simple

partidos que aquí en vitoria prenden la mecha cuando salen de la confortabilidad de este parlamento tratan de apagarla como

pueblos y ciudades en las que gobiernan asumir como propio este ataque

supone este proyecto de ley para la gestión de sus y qué lectura hacemos desde el partido popular ciudadanos pues son varias y ninguna de ellas

es un proyecto de ley tramposo es un proyecto de ley indigno porque ustedes sortearon el control de la comisión de gobiernos locales

encargado de alertar sobre aspectos que pudieran vulnerar la autonomía municipal presentando un texto y ahora por la puerta de atrás sin retorno posible

una enmienda que cambia sustancialmente el espíritu de ese texto

este proyecto de ley tramposo este proyecto de ley indigno nos deja otras lecturas no menos preocupantes como el poco respeto que tienen ustedes por nuestro entramado institucional al que no dudan en sustraer competencias con tal de reforzar su poder y eliminar obstáculos en su camino

este proyecto de ley supone una quiebra en la confianza una quiebra en la lealtad interinstitucional y abre el camino a la duda de qué será lo siguiente

este proyecto de ley supone asestar una puñalada al corazón de la autonomía municipal y dar paso

que tanto ansían si lo que ustedes querían quieren es una ley para aplastar cualquier posible discrepancia que les pueda incomodar díganlo claramente y no se escondan detrás de la puerta

y presenten de nuevo un proyecto de ley que recoja todas sus pretensiones debatan abiertamente lo que pretenden hacer sin atajos sin triquiñuelas pero sobre todo no humillen

como la mejor fórmula de gestionar los intereses de los ciudadanos y les voy a decir una cosa si ustedes quieren hablar de proyectos de interés público superior tráiganlo a debate

lo debatiremos influiremos y mostraremos nuestra opinión sobre ellos que seguramente es más fácil venir negociar y acordar

pasa por su validez jurídica y la validez jurídica está determinada por el qué y el cómo se aprueban las normas el qué

lo dictado por otras normas que se consideran superiores en este momento y el cómo que el procedimiento seguido sea el adecuado y el correcto y en torno a estas dos cuestiones esta

bastantes dudas me refiero en primer lugar a lo que se contiene en la ley siete barra mil novecientos ochenta y cinco que es la reguladora de las bases del régimen local ya se sabe se ha nombrado también que aquí se establecen las competencias municipales y entre ellas en el artículo veinticinco se recoge la ordenación gestión ejecución y la disciplina

en el artículo veintisiete de esta misma ley también se prevé la posibilidad de que

puedan delegar en los ayuntamientos competencias diversas al contrario no se recoge claro cuando

se pretende decidir que se quiere construir por ejemplo

o una planta solar de quince hectáreas en suelo rural alavés por cierto de la mano del grupo mondragón ekiola o un parque eólico

también no solamente se está abriendo la mano poniendo fácil el negocio a las empresas amigas se está también y en este caso es lo que queremos comentar se está metiendo la mano en la autonomía y en las competencias municipales y es que tenemos que recordar que fue precisamente

otros contextos muy concretos anteriormente fue el plan general del ayuntamiento de vitoria gasteiz el que detuvo precisamente el proyecto de los pozos de gas de subijana

esta circunstancia que decidieron hacerlo de una

y que se han sacado así digamos de la manga esta enmienda para acabar con la posible resistencia de los municipios donde no se les permite imponer

esto nos sugiere una pregunta y es cómo vamos a explicarles o cómo les van a explicar mejor dicho a la ciudadanía vasca que las elecciones municipales no sirven para nada porque gane quien gane

los van a decidir desde lakua pero hay más cosas también para criticar o para echar en cara a

y me refiero al proceso por el cual se ha introducido

autoenmendarse es una posibilidad lógica

legítima absolutamente eso sí las autoenmiendas a un proyecto de ley tienen depende su sentido de no solo de su cantidad sino sobre todo de su contenido y en este sentido

que las enmiendas deben versar siempre sobre la materia a la que se refiere el proyecto de ley que se trata de modificar y en este caso

no se puede sostener que se cumpla con esta jurisprudencia del tribunal constitucional porque cuando eudel o la cojua que se han nombrado antes

en torno a la ley de administración ambiental no se expresó teniendo en cuenta esta enmienda sesenta y uno que como se ha dicho altera

desde luego entre otras cosas la ley de ordenación territorial y para cambiar esta ley de ordenación territorial lo que se tenía que haber hecho correctamente es un proyecto o proposición de ley de reforma de la ley de ordenación territorial y en ese caso

asesora hubieran emitido un informe al respecto

el artículo noventa de la ley de instituciones locales de euskadi para analizar si se vulneran las competencias municipales

desde elkarrekin podemos ezker anitza hemos registrado más de veinte mociones en diversos ayuntamientos pidiendo por una parte que el gobierno retire esta enmienda sesenta y uno y por otra parte al menos que se permita que eudel se pronuncie al respecto

en esta petición es precisamente el contenido de la moción que se aprobó en irún

con los votos favorables por cierto del partido socialista de euskadi e incluso

nacionalista también eso es una moción que se ha aprobado también en otros ayuntamientos también aquí en gasteiz en vitoria

antes de que el eco de estas mociones lleguen a este parlamento ustedes han decidido aprobar la ley el próximo nueve de diciembre

las navidades las fiestas pues bueno que silencien que disimulen este

defendatzen hori ez dugu benetan ulertzen y una cuestión también que nos sugiere toda esta operación este es realmente el modelo territorial del pnv no financiar a los municipios y decidir desde lakua

para ejecutar lo que se decida desde la gran matriz que es lakua esta es la defensa del autogobierno la defensa del derecho a decidir qué quiere hacer el pnv

propio pnv y las élites económicas a las que representa las que puedan hacer y deshacer en euskadi a su antojo ese es el modelo territorial de autogobierno que quieren para euskadi cuando la ciudadanía se moviliza

es porque saben temen como nosotras que se van a empezar a meter vertederos e incineradoras donde quieran

como lo hacemos nosotras que van a declarar proyectos de interés público superior a todos los parques eólicos y solares que quieran

y ya veremos también en cuántos de ellos están precisamente iberdrola grupo mondragón con los cuales colaboran en las sociedades como o ekiola para sacar adelante

bien por todo esto que he expuesto hemos firmado la enmienda transaccional en la que se solicita la retirada del sesenta y uno la participación de los representantes de los municipios y

vehemencia que pone defendiendo los temas aquí a veces es que me recuerda a aquel jesuita

cómo teniendo siempre el la razón el mundo se empeñaba siempre en estar equivocado vayamos un poco a la cuestión en concreto

en el calor de la batalla hemos puesto todos los papeles encima de la mesa y yo no sé si los tenemos bien ordenados así que sí que me gustaría empezar

de cómo han venido de dónde venimos y hacia dónde vamos porque no podemos olvidar que hoy lo que se está debatiendo aquí de una forma un poco rara

es una enmienda una ley todavía digamos que la ley viene la semana que viene a pleno pero hoy estamos aquí en forma de moción debatiendo la misma estamos hablando de un proyecto de ley que su andadura reciente porque tiene una etapa anterior en la anterior legislatura

tras un periodo de comparecencias y de diferentes prórrogas todos los grupos presentamos nuestras enmiendas al proyecto durante el mes de junio

por los grupos socialistas y nacionalistas vascos se registraron el día quince del presente año es decir hace

el diecinueve de noviembre se reúne en la ponencia para el estudio de las enmiendas y el ponente de eh bildu usted señor otero abandona la reunión por su disconformidad con una de las enmiendas presentadas y creo que este es un dato que por lo menos merece la pena dejar constancia en el diario de sesiones el representante de eh bildu se levanta de la mesa y se va y justo

sino que paralelamente se presenta una cascada de emociones en los ayuntamientos donde bildu tiene representación

y a consecuencia de la misma pues estamos hoy aquí debatiendo esta moción

debemos de sacar del debate de hoy desde el primer momento eh bildu

más que poner el ventilador en marcha buscar los focos de atención que políticamente más le convienen pero yo creo que la conclusión más importante es que en el debate de hoy no tiene el debate de hoy no tiene como finalidad la búsqueda de ningún acuerdo

y nadie se va a mover ni un milímetro hoy la oposición sabe que el que se mueva

y desenfocado pero vayamos al tema en cuestión que

todos los grupos todos asumimos el gran reto que tenemos ante nosotros con la lucha del cambio climático contra el cambio climático hitz polit asko baina konpromiso lotesle gutxi

que quede clara la magnitud del problema y podría seguir citando y citando frases no son mías

pero lo curioso es que yo creo que la gran mayoría de los grupos

la definición del problema yo creo que estamos de acuerdo en la importancia del reto que tenemos delante y esa es la cuestión que el debate que nos trae hoy aquí

si no perdemos de vista el contexto general el reto es brutal por primera vez en la historia de la humanidad tenemos que tomar decisiones en nuestra escala temporal histórica que afectarán al tempo geológico me explico hablamos de magnitudes que se escapan a nuestra imaginación decisiones que deberemos de tomar en menos de diez años

miles de años en la historia del planeta y la urgencia es total y vuelvo a citar al señor otero solo estamos comenzando a ver los primeros destellos de una gran tormenta sin embargo en este contexto nuestro ordenamiento jurídico no está preparado para el reto que se nos presenta

a todos los niveles desde europa españa y lógicamente también en euskadi y ustedes lo saben

porque los proyectos para avanzar en sostenibilidad y los objetivos a corto plazo para la lucha contra el cambio climático no pueden esperar a los plazos que requieren los procedimientos de la normativa urbanística y del planeamiento territorial

a cumplir con los objetivos medioambientales y ese es precisamente el objetivo que pretende la enmienda presentada por los grupos socialistas vascos y nacionalistas vascos

que haga una pequeña referencia aunque sea un breve minuto al famoso y tan cacareado

en mi patio trasero los amantes de la literatura sabemos que cuando al abrir una novela comienza con los buenos muy buenos y con los malos muy malos lo mejor que se puede hacer es cerrar el libro y no seguir leyendo cualquier simplificación de los fenómenos sociales

en el tintero los elementos necesarios para poder comprenderlos

estabilidad en un mundo que parece escurrirse entre nuestros dedos una vez más cuando parecía que nos sabíamos las respuestas nos vemos obligados a tener que cambiar las preguntas

de décadas de una doctrina económica basada en el consumo desmedido y en la quimera de que unos recursos parecían infinitos de que los recursos parecían infinitos

bajar el volumen de la música y dar por terminada la fiesta no podemos criminalizar a quienes con los datos que tienen sobre la mesa

pero la realidad es que este no es un reto local las respuestas tenemos que buscarlas en procesos globales esto no va de pueblos naciones ni estados quizá sea la primera vez que el reto al que nos enfrentamos lo tenemos que enfrentar

todos nuestros objetivos todos la descarbonización de la economía la necesaria electrificación de buena parte de nuestro consumo energético incluso la tan cacareada soberanía energética de la que tanto hablan algunos el aumento de la presencia de energías limpias dentro del mix energético de nuestra disposición la implantación de una economía circular que permita la optimización de los recursos

todos ellos todos estos retos son comunitarios retos que no solo hacen pequeño los límites de nuestros municipios

han amenazado los límites nacionales y a veces han puesto incluso en cuestión los límites continentales insisto

la enmienda es inseparable de sus circunstancias intentar debatir sobre el contenido de la enmienda desgajándola de su contexto no es más que un juego de manos un intento de hacer trampas al solitario quisiera terminar dedicándole también unos minutos a desmontar alguno de los mitos que en las últimas semanas se han venido construyendo en torno a esta enmienda

se trata de una figura que está generalizada en españa prácticamente en todas las comunidades autónomas tienen figuras similares segunda es una medida con paralelos en otros estados europeos

el ordenamiento territorial a las nuevas realidades herramientas como el plan territorial sectorial de infraestructuras de gestión de residuos

son fundamentales pero son procesos largos años de tramitación y euskadi necesita una figura ágil garantista y tasada que permita que la lucha contra el cambio climático sea exitosa

de los proyectos de interés público superior reside en el consejo de gobierno pero antes el proceso es participativo y garantista no es arbitrario ya que se solicita numerosos informes entre ellos un informe de impacto ambiental y un informe vinculado a la comisión de ordenación del territorio del país vasco la autonomía municipal no queda limitada

o no de estos proyectos ya que son consultados y pueden realizar sus alegaciones

lo dije en la defensa de la ley de conservación del patrimonio natural la ciudadanía

de nosotros que seamos capaces de tener altura de miras necesarias para afrontar los grandes retos de futuro no perdamos el tiempo una vez más en debates estériles

el otro día en la comisión el otero dijo se nos ha impedido a los grupos ejercer nuestros derechos constitucionales

una delimitación material entre enmienda y proposición de ley

la mesa de la cámara contará con un amplio margen de valoración eta puntu honetara iritsita

enmienda sesenta y uno no pretende modificar el código penal de ninguna manera es verdad que sí que pretende modificar la ley de ordenación del territorio también es verdad que tenemos entre otras otra enmienda que no es la sesenta y uno que es la sesenta y cinco que pretende modificar

izan duena baina klaro hor ez dago konkordantziaren inolako arazorik porque esto de la concordancia material y de la creación de

hori eso va por barrios pero vamos a dejarnos de disquisiciones jurídicas que si tienen que venir ya vendrán y por cierto el señor fernandez de betoño en la interpelación que le hizo la señora consejera aludía

al consenso que logró la ley de ordenación del territorio he estado echando un vistazo al debate de esa ley el año noventa

pues por ejemplo no contenía a herri batasuna que andaba a otras cosas y ni se molestó en participar en la ponencia de una ley que ahora mira por dónde consideran totémica tampoco el consenso alcanzaba a euskadiko ezkerra que por cierto cuyo parlamentario hizo un comentario que a raíz de lo que ha dicho

a cuenta de que todo esto viene por lo de zaldibar el año noventa

si el gobierno tiene problemas para abrir un vertedero el año noventa que se busque la vida que no nos pida sopitas aquí en el parlamento y en aquel debate por cierto ea lamentaba que las directrices de ordenación del territorio quedaran en manos del gobierno y no en las del parlamento así que

así te puedes tirar treinta años en la oposición pero no cambias las condiciones de la gente o no mejoras la vida de la gente y hay que arriesgar

falta tratar la emergencia climática como lo que es la emergencia climática

argudioei buelta emanez kasuan udal autonomiaren argudioa el partido nacionalista vasco no desmonta la autonomía municipal desde siempre hemos trabajado mucho mucho más que la izquierda abertzale en la institucionalización a todos los niveles de este país y no creo que haga falta poner ejemplos

imponer nada sino aplicar la mayoría democrática para intentar soluciones efectivas a las urgencias colosales que tiene esta parte de euskadi

yo le tengo por una persona atenta y para nada despistada yo creo que hoy usted se estaba haciendo el despistado no creo que esté despistado esto no va a solucionar ni el cambio climático ni la transición energética ni nada esto va de estamos hasta las narices de que se nos paren proyectos por el planeamiento urbano

los proyectos porque la ordenación del territorio es una traba y esto va de que nosotros queremos hacer lo que queremos hacer donde queremos hacer cuando queremos hacer

para eso dotamos a la consejera de medio ambiente de la capacidad de decidir lo que es el interés superior no como el resto no como el resto

interés social medioambiental en el que puede caber todo lo que se le ocurra a este gobierno y si el problema es de residuos solucionemos la cuestión de los residuos

poner una planta un lugar de tratamiento de residuos

y tener que ponerlo en los lugares donde la gente se resiste sabemos muy bien lo que es ese problema

estábamos dispuestos desde el minuto uno no habéis querido no habéis querido eta alonso jauna

de una ley técnica de la ley de administración ambiental que es una ley técnica y que la hemos convertido en una ley de debate político pero es que no hemos sido nosotros es que cuando se ha abierto el proceso de negociación de las enmiendas

pero que su límite lo que yo pedía en realidad era que este parlamento pudiera opinar pudiera legislar sobre esos proyectos de interés superior sí ahí es cuando se cerró la negociación cuando

le mostré mi interés en negociar sobre todo porque los proyectos de interés superior se han negociado en otras comunidades como una ley los parlamentos

las voces de los ciudadanos que han comparecido en esas ponencias para legislar a ese respecto lo que ha sucedido aquí es que

se ha saltado cualquier informe eudel no se ha pronunciado y es lo que realmente se pide que se dé una oportunidad a eudel a la cojua a pronunciarse

se lo propusimos y ahí fue cuando se cerraron las negociaciones sobre la enmienda sesenta y uno

que nos trae hoy aquí a debatir sobre la ley de administración ambiental la ley de administración ambiental ha dejado de ser una ley técnica que iba a luchar junto con la ley

por la conservación del patrimonio por la lucha contra el cambio climático sin embargo los proyectos de interés superior que son necesarios seguramente en el ámbito de los residuos sí podemos entenderlo tenemos un problema en el país vasco con los residuos industriales vamos a solucionarlo pero no por la puerta de atrás vamos a traerlo a este parlamento

es eso ustedes no han querido acordar en ese aspecto tienen miedo a negociar ese aspecto vamos a negociarlo se les ha tendido la mano les tendemos la mano traigan a este parlamento una ley reglamentar los proyectos de interés superior sacaremos algo en claro y ayudaremos al cambio climático en tanto en cuanto podamos hablar y debatir sobre ello y legislar sobre ello no por la puerta de atrás no es una jugada bonita saben ustedes que en el juego y en la mesa está

los grupos parlamentarios que hemos suscrito la enmienda transaccional hemos explicado bastante claro por qué nos criticamos y nos oponemos a la enmienda sesenta y uno de la ley de administración ambiental

y por el cómo no he visto en las argumentaciones de los grupos que sostienen esta decisión de la enmienda sesenta y uno

que contraponga realmente a nuestros argumentos el señor alonso del partido socialista de euskadi yo creo que en una

de alguna manera con una excusatio non petita accusatio manifiesta nos hablaba de que no iba

de entrar en el fondo de la cuestión pero lo cierto es que no ha entrado no ha entrado ha hablado durante diez minutos de muchísimas cosas pero no ha rebatido en ningún momento el fondo de la cuestión por lo tanto a mí eso lo que me hace pensar es que no tiene argumentos para rebatir el fondo de la cuestión y eso me preocupa

lo ha dicho similares bueno es posible que tengan instrumentos similares en todo caso serían similares y fíjese otra cosa la enmienda sesenta y uno en vez de enmienda hubiera estado inserta en el proyecto de ley o hubiera formado parte de otro proyecto de ley expresamente dedicado a eso tal vez hasta hubieran podido venir a comparecer todas esas comunidades autónomas que tienen esos instrumentos las hubiéramos llamado

en qué consiste cómo funcionan qué problemas causan etcétera pero no ha podido ser arrizabalaga andreak

bien por responder a algunas de las cuestiones

sinceramente o sea ha visto usted una pancarta ha pegado dos codazos se ha metido ahí creyendo que está en la plaza de colón y yo no sé si realmente si realmente usted sabe quiénes son sus compañeros de pancartas y no sé si usted sabe realmente qué es lo que reivindican

yo no estaré de acuerdo y me parece que posiblemente es puro oportunismo pero como partidos de izquierdas que son yo les reconozco

es qué hace usted metida en esa pancarta posiblemente sea la nueva derecha del señor casado sí que me gustaría

su enmienda a la moción dice el parlamento se opone a cualquier proyecto que pueda vulnerar la autonomía o competencia de las entidades locales o de los municipios me gustaría

nueve barra noventa y cinco de medidas de ordenación del territorio suelo y urbanismo de madrid

aprobadas por el gobierno del señor ruiz gallardón del partido popular

que establece que las obras promovidas directamente por la administración pública no estarán sujetas a licencia urbanística aprobadas por el señor fraga iribarne del partido popular por cierto

que está negociando y está tramitando una nueva ley que incluye una figura como esta

qué opina usted de la ley dos barra dos mil uno de cantabria que regula la figura de proyectos singulares de interés regional

del partido popular qué opina usted de la ley foral treinta y cinco barra dos mil dos de veinte de diciembre señor otero apúntelo que luego voy con usted

sesma del partido popular qué opina usted de la ley cinco barra dos mil seis de ordenación del territorio y urbanismo de la rioja

del partido popular y la ley cinco barra dos mil catorce de ordenación del territorio y urbanismo y paisaje de la comunidad valenciana aprobada por el señor fabra del partido popular

que considera actuaciones de interés regional aprobada por el señor garre del partido popular señora

dos de cada tres leyes que incluyen las figuras que según usted

vulneran la autonomía y competencias de las entidades locales o los municipios dos de cada tres leyes han sido aprobadas por el partido popular en españa y ahora viene usted

señor otero volviendo un poco a la ley foral treinta y cinco barra dos mil dos ustedes créanme yo sé que usted me ve con buenos ojos pero yo soy despistado

pero no me consta ninguna declaración porque usted recuerda que ustedes estuvieron en el gobierno en aquella comunidad autónoma

indagando en la hemeroteca ninguna declaración de la consejera de desarrollo rural administración local y medio ambiente ninguna declaración de la señora elizalde diciendo que esa ley

no diciendo ninguna ley no dijo en ningún momento que si se metía la mano en el bolsillo de ningún municipio etcétera etcétera por lo cual yo

y aun siendo despistado y de digestión lenta por lo menos me suele gustar de vez en cuando plantear diferentes escenarios me planteo tres uno que llegaran ustedes al gobierno y no sabían que la ley estaba opción que obviamente descartó la segunda

lo sabían pero tampoco les molestó en el desarrollo de su gobierno y estuvieron cuatro años y así se la encontraron y así la dejaron que ustedes lo sabían posiblemente no les gustaba pero priorizaron el necesario equilibrio para mantener un gobierno de coalición marquen ustedes marquen ustedes la casilla que les parezca más oportuna y quédensela quédensela para su propia conciencia yo

proyectos de interés público superior

de promoción pública enmienda sesenta y uno podemos arrebató el otro día según vimos la bandera verde a eh bildu por su defensa del patrimonio natural y de las

los ayuntamientos están obligados a modificar su plan general para acoger en el mismo el plan natural no sé si eso atenta también

y por cierto esto es un golpe al modelo territorial de euskadi y la agencia de la biodiversidad que plantearon como enmienda a la ley de patrimonio natural que el señor otero

se lo puso en evidencia que hacían desaparecer las

a lo mejor es que las diputaciones tampoco les gustan tanto no lo sé porque da la impresión de que ustedes aplican unos u otros criterios en base a lo que les guste o les disguste

que nos ha lanzado un listado de cosas

gu alde gaude pts de renovables muy participativa por cierto se está tramitando

esto es lo que pasa así que no nos hagamos trampas en el solitario los planes marcan el lugar más idóneo para algo y luego hasta la fecha

por lo menos hasta ahora no lo han estado de todas maneras es voluntad manifestada de este gobierno seguir con la planificación no solamente el de renovables

consejero consejeros señorías bien después de un debate que aventura bastantes problemas

vamos a pasar a uno que es motivo de alegría y de buenas expectativas y desde luego yo me voy a poner en la pancarta del agradecimiento

en la pancarta del agradecimiento por qué porque

ha donado doscientos ochenta millónes de euros al ministerio de sanidad para la compra de diez equipos de protonterapia para el tratamiento contra el cáncer estos equipos serán los primeros destinados a proporcionar los tratamientos más avanzados contra el cáncer que pertenezcan al sistema nacional de salud hasta el momento los dos únicos equipos existentes en el país en españa pertenecían a dos centros privados

y a la clínica universitaria de navarra el país vasco será una de las comunidades autónomas receptoras de la importante donación y la consejera de salud ha participado con la ministra de sanidad y de representantes de la fundación ortega y otros representantes autonómicos

en la moncloa del acuerdo de donación un equipo de veintiocho millónes de euros donados a nuestra sanidad

luego me referiré brevemente a la protonterapia pero esta técnica lo que hará posible es salvar vidas de cientos de personas y ofrecer y de miles de personas y ofrecer durante muchos años y ofrecer a miles de pacientes una posibilidad de curación con tratamientos más cortos menos agresivos y con una mejora importante en su calidad y además permitirá y servirá para tratar a enfermos oncológicos de navarra de la rioja de cantabria de las provincias de burgos y soria en castilla león lo que hace

tan complicados para la salud se reciben con especial la alegría noticias como la que se dio a los vascos el pasado mes de octubre con esta donación del equipo de protonterapia para nuestra sanidad pública y vuelvo a decir una magnífica noticia para nuestro sistema de salud y un impulso

sobre todo un impulso esencial para el plan oncológico vasco dos mil dieciocho dos mil veintitrés que presentó a este mismo parlamento

en este parlamento el plan oncológico vasco dos mil dieciocho dos mil veintitrés y además estos días

y vemos cómo esta nueva donación enriquece ese instrumento la cuestión del abordaje oncológico este equipo y se instala en todas y cada una de las líneas de actuación oncológico vasco es decir fundamentalmente en la asistencial pero en muchas otras más y sobre todo en la humanización de la atención oncológica fundamentalmente

el plan habla de tres elementos clave e interdependientes que

intersectorial y un cuarto complementario el plan habla de que se asienta un modelo asistencial bueno pues esta donación

asistencial con una infraestructura de estas características que va a hacer lo que dice el plan reducir los tiempos de diagnóstico y tratamiento del cáncer y concentrar el tratamiento de casos de cáncer relativamente infrecuentes y en aquellos en que el resultado está condicionado por el volumen de casos que se atienden es decir a avanzar en la capacidad de ofrecer modelos organizativos además con esta nueva tecnología en relación a lo que el plan oncológico establece

hay que recordar que el propio plan oncológico ya hablaba

de que nada es posible sin el apoyo de las tecnologías de las nuevas tecnologías que permitan ofrecer una atención efectiva y segura a las personas con cáncer también el plan oncológico vasco recuerda cómo se contó

que permitió renovar allá por dos mil dieciocho dos mil diecinueve cinco aceleradores lineales para la radioterapia y un mamógrafo para diagnóstico es decir

que vino precisamente a dar el punto de salida a lo que era la innovación

una segunda fase también recuerda al plan oncológico otras cuestiones la segunda clave era

si mejoramos las tecnologías y el sistema asistencial habrá que mejorar y se mejorará el sistema de información a los pacientes pero la tercera clave de las tres que menciona el plan oncológico vasco es la medicina personalizada y de precisión que sabemos que se concreta

los avances últimos en relación con la atención oncológica y que se concreta precisamente en la capacidad asistencial que infraestructuras de estas características van a conseguir

es decir además de la medicina personalizada de precisión además del modelo asistencial

que surgirán después de la implantación de esta nueva tecnología cercana cada vez más al paciente además además está la investigación y la innovación y la capacidad de formación de los oncólogos en relación alrededor de esta nueva

la protonterapia es una modalidad de radioterapia basada

lo que permite liberar la radiación de forma más localizada

que produce menos efectos secundarios con la misma tasa de curación su gran ventaja es que logra irradiar menos tejido sano que rodea al tumor lo que hace especialmente útiles en tumores localizados cerca de estructuras y órganos muy sensibles a la radiación como tumores cerebrales o localizados en la columna vertebral el globo ocular además también es especialmente útil en el cáncer infantil debido a que los órganos de los niños y las niñas en plena formación son más sensibles a la radiación pues bueno en todas estas cuestiones va a avanzar el equipo que la fundación

a la sanidad pública vasca como decía antes hace dos años el centro de protonterapia de quirónsalud en madrid trató al primer paciente en españa con esta terapia ahora este grupo privado y la clínica de navarra son los únicos lugares de españa donde se puede recibir esta cura por lo que los pacientes necesitados de este tipo de tratamiento

clínicas privadas o debían de marcharse al extranjero que tantos ejemplos ha habido

durante tanto tiempo o sea que se avanza socialmente de una manera impresionante

asienta fortalece la sanidad pública vasca tenemos que decir que desde la sociedad de oncología

radioterápica se ha recibido esta noticia con una total satisfacción destaca cómo los protones a diferencia de los electrones

ellos dicen más elegantes que permiten depositar esa dosis de radiación justo en el tumor lo que hace especialmente bueno como decía antes para los niños las niñas

con órganos muy sensibles y depositar la energía con tal fidelidad que no se dañan

histórico en nuestra sanidad este equipo que la fundación

se lo queremos agradecer y yo creo que este parlamento en nombre de la sociedad vasca se lo tiene que agradecer se sigue llamando también

como la radiación del futuro tenemos que recordar que han sido diez máquinas

las dos existentes en españa las que ahora tendremos en españa doce que

donde ahora hay treinta en funcionamiento siete de ellas en alemania es decir nosotros vamos a superar a alemania también en este tipo de abordaje

oncológico y se estima que el cinco o diez por ciento de los pacientes oncológicos requerirán ahora mismo radioterapia con protones por lo que se cree que la donación de

se va a atender a toda esa masa de población que va a requerir el tratamiento oncológico además es que en cuanto a la importancia económica de la donación se trata de tratamientos muy costosos por qué porque la inversión

pero de todas maneras una vez hecha servirán para tratar a muchísimos pacientes durante muchísimos años

hasta ahora lo que hace que este tipo de inversiones compensan porque ahora no van a estar sufragadas por la sanidad pública ni por los presupuestos van a estar sufragadas por la fundación

que hay que destacar ya hemos recordado que las máquinas se instalarán en el país vasco cataluña galicia andalucía comunidad valenciana madrid y canarias

asistencial de lo que desde luego están bien preparadas las comunidades autónomas receptoras por lo menos la comunidad autónoma vasca como así lo ha expresado la consejera

en la sanidad vasca y en concreto la radioterapia vasca da un paso de gigante con el equipo de

donado por la fundación amancio ortega en relación con la asistencia oncológica además paralela a la formación de oncólogos de enfermería oncológica que también se va a ver muy reforzada alrededor del uso de este equipo

nos ayuda a cumplir las previsiones de nuestro plan oncológico de euskadi y es una donación mirando a las personas y mirando a la salud por eso hemos presentado

que busca que la sociedad vasca a través de este parlamento agradezca este importante paso en nuestra salud en nuestro

bien señor amancio ortega y el grupo inditex

del partido popular a raíz de una vez más las donaciones sanitarias

lo que muchos consideran como el señor barrio un ejemplo de filantropía y generosidad en nuestra opinión se desvanece si hacemos un breve repaso por la historia de ese gigante textil desde la explotación de costureras gallegas a la explotación de niños en bangladesh así es como amancio ortega ha llegado a ser uno de los capitalistas más ricos del mundo

a nivel mundial en los talleres contaminantes de indonesia e india desde galicia hasta brasil

encontramos ejemplo del modelo de negocio que ha hecho prosperar amancio ortega precariedad

elusión fiscal y acuerdos con fiscalías de todo el mundo para tapar sus vergüenzas hoy el señor barrio del partido popular nos propone una vez más

dar las gracias a este capitalista por sus donaciones limosneras que solo buscan blanquear su imagen y que de paso le desgravan impuestos el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi están de acuerdo con darle

sobre todo están de acuerdo con que este parlamento le dé las gracias nosotros no

si acaso lo único que tenemos que decirle son dos cosas que pague sus impuestos sin triquiñuelas

a la que el pertenece la de quienes concentran en unas pocas manos los mayores patrimonios del mundo a costa de la pobreza de una inmensa mayoría

al que le sobran los millónes porque ha decidido hacer una donación

cuando sabemos de los numerosos casos de explotación laboral y explotación laboral extrema que hay detrás de sus negocios en todo el mundo

nosotros pensamos que no y rechazamos categóricamente que este parlamento

servil y vergonzante dando las gracias a quien gasta cientos de millónes en comprar yates de uso personal a través de empresas en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos en nuestra opinión la obligación de este parlamento es trabajar para que la administración pública disponga de los recursos públicos necesarios para una sanidad pública de calidad

no debe depender de la buena o mala voluntad de una persona

era necesaria osakidetza debería garantizar que estuviera en la sanidad pública

públicos un sistema público universal se financia con los impuestos que las personas y empresas pagan porque es su obligación y no con caridad porque es el sistema que redistribuye la riqueza la sanidad pública debe tener una financiación suficiente y ello significa impuestos suficientes y una recaudación progresiva situación que no se da en nuestro país es conocido conocemos todos el enorme diferencial en presión fiscal por debajo del promedio de la unión europea que tenemos en euskadi

y los trabajadores superan de media el veinte por ciento en el irpf los impuestos al trabajo

son más bajos en nuestra opinión las donaciones privadas son muy frecuentes en países

o baja y con ello con servicios públicos insuficientes en cobertura y en medios un ejemplo paradigmático sobre todo si hablamos de sanidad y de salud podría ser

digno de llamarse así en cambio hay otros países en los que hay un potente estado de bienestar con potentes servicios públicos de cobertura universal y medios suficientes allí hay una importante presión fiscal y sobre todo de carácter realmente progresivo y allí justamente

apenas se dirigen a programas de ayuda internacional por lo tanto para nosotros señor barrio la pregunta es cuál es el modelo de sociedad que queremos el apoyo a las donaciones viene siempre de la mano de los partidos neoliberales como el suyo de los grupos empresariales

en toda europa no somos una excepción nosotros no queremos ese modelo el empresario gallego al que nos proponen dar las gracias recuperará por la vía de las desgravaciones fiscales

más de un tercio del dinero que las comunidades en nuestro caso euskadi tendrán que adelantar para comprar los aparatos de diagnóstico y tratamiento del cáncer

recuperarán más de un tercio del coste del programa vía desgravaciones de manera que una tercera parte de esas donaciones aproximadamente en realidad

en matemáticas pero casi cien millónes de euros los va a pagar

a dónde se destinan esos recursos porque es una donación

en españa este señor con sociedades pantalla en malta por ejemplo por sus megayates esto sale a cuenta o a devolver a las arcas públicas no tenemos acceso a la declaración de renta del señor ortega y desconocemos cuántas empresas tiene fuera de españa y dónde las tiene sí conocemos que pontegadea inversiones la sociedad patrimonial a través de la cual gestiona tanto su participación personal en inditex como su negocio inmobiliario que no es menor herramientas que utiliza para pagar lo menos posible caso conocido recientemente por la prensa es el de la compra de un yate de noventa y cinco millónes de euros

para una operación que según un portavoz de su empresa no tenía una motivación fiscal de privacidad nos toman por imbéciles parece que esa privacidad que requiere para la compra de un yate no la requiere para sus donaciones y parece que tiene

de hacerle publicidad con iniciativas como esta ese es en nuestra opinión el objetivo de esas donaciones propaganda

donaciones condicionadas condicionadas y finalistas en este caso a la tecnología que ha descrito el señor barrio para el tratamiento

los intereses del donante predominan no se priorizan los intereses generales del sistema sanitario ni las necesidades de salud más apremiantes de la población

nosotros pensamos ya lo dijimos una vez en este parlamento que es peligroso que particulares

se condicionan intereses estratégicos del sistema sanitario en base a intereses particulares hay muchos intereses detrás de estas donaciones y tenemos que señalarlos

que pague sus impuestos como corresponde y que no organice campañas de publicidad nosotros pensamos que no se necesitan donaciones a la carta sino impuestos justos que garanticen unos servicios públicos en este caso de sanidad

suficientes y para eso como decía los impuestos se deben modificar tiene que haber una reforma fiscal

y por lo tanto justa de todas las personas una vez se garantice esta equidad fiscal que asegure la contribución

que no sucede nada si alguien quiere contribuir con una donación a la sanidad pública siempre que sea incondicionada y pueda ser utilizada por las administraciones de acuerdo con las necesidades

no tiene ninguna lógica más allá de la lógica del mercado y de algunos intereses particulares y nosotros señor barrio tampoco podemos ignorar a la hora de valorar lo que nos propone

arrastra desde sus inicios denuncias y condenas por explotar a sus trabajadoras y trabajadores en todos los rincones del planeta así como por el uso de materiales contaminantes voy a poner solo un ejemplo inditex tuvo que pagar cinco millónes de reales brasileños casi un millón y medio de euros en brasil tras llegar a un acuerdo con la fiscalía

sin papeles trabajaban explotadas producían prendas en talleres subcontratados de sao paulo en total hasta treinta y tres talleres subcontratados trabajo esclavo con jornadas de hasta dieciséis horas menores de edad trabajando espacios minúsculos se les

el baño el objetivo de estas donaciones es lavar su imagen que es la imagen de evadir impuestos hasta seiscientos millónes desde el año dos mil dieciséis

las gracias sobre todo nos preocupa que sea el parlamento el que le dé las gracias

aquí hablamos de dos modelos de sociedad porque

de servicios públicos bajo mínimos nos trae aquí una loa a un donante que sorpresivamente como ya se ha mencionado por un compañero por el señor hernández previamente ha sido recientemente noticia

no porque le guste malta sino porque quería pagar menos impuestos por un superyate que se ha comprado nuevo y el que ya fue noticia en su momento también por un informe que presentaban los verdes

según el cual el grupo empresarial del que es dueño esta persona

alrededor de setenta y cuatro filiales en paraísos fiscales o en plazas

el dotar a nuestro sistema de salud de las mejores herramientas de las mejores maquinarias y de los mejores profesionales no debe ser una prioridad a financiar por los presupuestos públicos

que tenga que venir una donación para que mejoremos el tratamiento de miles de personas enfermas

estamos hablando del derecho a la salud y la verdad creo que eso es un tema serio

nosotras defendemos un modelo redistributivo que funciona basado en la solidaridad en la justicia

la administración debe decidir en qué se emplea el dinero

es la administración pública la que tiene que decidir en qué se emplea el dinero decía antes en mi intervención que sé que todos décimos y en este parlamento muchas veces es hacen alegatos en defensa del sistema público de salud

pero la realidad es que del dicho al hecho hay un trecho y aquí también influye una vez más el modelo cada uno el modelo de sociedad que cada uno de nosotros y nosotras defendemos porque el grupo proponente que en más de una ocasión ha utilizado

para ensalzar el modelo fiscal por ejemplo de la comunidad de madrid siempre olvida mencionar que en esas defensas que madrid es la comunidad que menos invierte y que por ejemplo para el presupuesto del dos mil veintidós madrid ha presupuestado setecientos ochenta y dos

menos del gasto real que realizó en el año diecinueve previo a la pandemia

que en madrid lo deben de fiar todo la mejora de la sanidad

y en definitiva todo va unido y eso es lo que siempre olvida el grupo proponente explicar que con su modelo hay menos dinero para la salud pública que con su modelo en definitiva

porque es necesario aclarar algunos aspectos de estas donaciones entre ellos los objetivos que se siguen y la pertinencia de la propia donación es necesario hacer pública una donación tienen las donaciones que ser finalistas ese es el debate que deberíamos de tener y en el caso que nos ocupa es evidente

las marcas comerciales que están detrás de esa fundación han conseguido una gran publicidad han conseguido asociar la marca comercial a la utilidad social y esto tiene un gran impacto en el mundo publicitario mayor que cualquier

es de sobra conocido el gran valor publicitario que tiene la vinculación con causas solidarias tanto sociales como

y eso también deberíamos de tenerlo en cuenta hoy en este debate dohaintza honek hainbat pertsonentzat onurak ekarriko dituela jakin badakigu baina hori

no he entendido desde que se presentó la necesidad de esta proposición no de ley

sobre la cuestión de las donaciones en inversiones de tecnología sanitaria que recogía un agradecimiento

con lo recogido en sus planes para seguir dando la mejor atención y por lo que hemos podido ver realmente las posiciones no han cambiado era bastante previsible

que no era necesaria una vez planteada este grupo nunca se va a oponer a debatir

de iniciativas y dicho esto también es verdad que yo no puedo compartir algunas de las cuestiones que he oído hasta ahora ni por el proponente ni por los enmendantes porque a mí me da la sensación de que se está haciendo un gran esfuerzo por una parte

malo algo que simplemente es bueno y por otra parte por ensalzar y beatificar algo que simplemente es bueno y ni una cosa ni la otra se hablaba ahora de que

el debate fuera el sistema posiblemente hoy tendríamos una transaccional con elkarrekin podemos y con eh bildu no ese no es el debate otra cosa es que otros estén utilizando ese debate pero ese no es el debate

y que yo vuelvo a decir no le veo la necesidad pero ya que nos lo

por qué digo que la donación es buena pues porque como saben la fundación amancio ortega y el gobierno de españa han suscrito un convenio

contar con diez equipos de protonterapia para un tratamiento oncológico y uno de ellos va a venir aquí a euskadi la fórmula y esto es importante es que el gobierno de españa los compra doscientos ochenta millónes en cuatro

generales del estado la fundación luego irá ingresando esa cantidad y al final

nos pone esas diez unidades nos pone a la altura de países como alemania como señalaba el señor barrio y damos un paso de gigante que nos pone a la cabeza junto con otras grandes naciones en la lucha contra

tecnología la protonterapia que permite un tratamiento muy eficaz en tumores de difícil acceso con una alta precisión y que acorta de manera

indicado para la población infantil yo

más allá de los prejuicios o las supravaloraciones de unos y otros me conformo con decir que es un hecho que es bueno

la pandemia me lo han oído en algunas ocasiones nos ha dejado muchísimas lecciones pero hoy podríamos traer aquí

público de salud la salud pública es el refugio seguro para los ciudadanos y para las ciudadanas

es un tesoro irrenunciable de nuestro estado de bienestar y si hablamos de servicios públicos

lógicamente un sistema público de salud no puede depender del altruismo claro que no claro que no pero es que eso no está en cuestión aunque haya quien hoy quiera sostener que sí

de la solidaridad de todos los ciudadanos y ciudadanas traducida en el sostenimiento de nuestro estado de bienestar a través del pago de los impuestos claro que sí y así es como les decía estamos de acuerdo en que el servicio público sanitario es un pilar del estado de bienestar y si estamos de acuerdo en eso también

y la asignación de recursos debe responder a criterios de eficacia y de equidad

las necesidades en materia de salud nunca nunca cuentan con los suficientes recursos disponibles siempre se necesitan más y en ese escenario es donde cabe plantearse si son compatibles o no con esos valores del sistema público sanitario

la posibilidad de recibir alguna donación privada que contribuya a mejorar esos servicios públicos y nosotros creemos que la respuesta es muy sencilla siguiendo un paralelismo que

yo le diría si la posible renovación de la tecnología de un sistema o la modernización del propio sistema o la construcción de un hospital depende exclusivamente de la buena voluntad

de un donante eso sería un síntoma pésimo e inaceptable

pero claro si al contrario al aceptar una donación privada un sistema sanitario público sólido y robusto como el nuestro puede liberar otros recursos

a intervenciones o programas que ya tiene identificados como de alta prioridad para poner en marcha y mejorar la salud de los ciudadanos pues adelante adelante

tratamos nuestro sistema público de salud no depende de donaciones nuestro sistema público de salud lo financiamos vía impuestos entre todos nuestro sistema público de salud

algo simplemente tan obvio como que esta donación

y de los presupuestos de euskadi con mayor inversión pública en sanidad de toda la historia con la mayor inversión pública de sanidad

en el plan inveat que es el plan de inversión en equipamientos sanitarios de alta tecnología sanitaria en el sistema nacional de salud

que este año se completará en el año dos mil veintidós una inversión total de más de setecientos noventa y seis millónes de euros para transferir a las comunidades autónomas

setecientos noventa y seis millónes a los que vamos a sumar los doscientos ochenta millónes

no depende esta innovación tecnológica de esa fundación sino que en los planes del gobierno donde quedan recogidos se añade

esta donación por lo tanto los socialistas defendemos un sistema de salud universal público de calidad equitativo un sistema público de salud

sino de la solidaridad de todos y todas reconvertida en la obligación del sostenimiento de nuestro estado de bienestar a través de los impuestos que pagamos los socialistas tenemos claro el modelo tanto que lo pusimos en marcha nosotros los socialistas tenemos claras las prioridades tanto

en hechos en los presupuestos con mayor gasto sanitario de nuestra historia allí donde gobernamos en españa y en euskadi

tecnología de lucha contra el cáncer que ayudará a miles de personas alguien en su sano juicio la rechazaría no

no por lo tanto agradecidos de la aportación y nosotros a lo nuestro a seguir consolidando un sistema público de salud universal

que si se encuentra con la posibilidad de sumar la mayor cantidad de recursos no lo duda lo acepta sin complejos porque tampoco tiene ninguna duda ni ningún complejo

es que dependa de nuestros impuestos nada más y muchas gracias eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak

agradecidos y esto le viene al dedo a la iniciativa que hoy nos trae el grupo popular ciudadanos en realidad es una cuestión que no debería ni debatirse porque el agradecimiento por supuesto tiene que estar ahí

actualizando sus equipos e instalaciones algo que es necesario para adaptarse a los continuos cambios sociales el señor amancio ortega empezó vendiendo pijamas y batas con tan solo catorce

disfruta de su beneficio pero arriesgó mucho para conseguirlo saben ustedes lo que es trabajar duro y arriesgar tu precaria economía para poder salir adelante

las máquinas donadas suponen un antes y un después para los enfermos que las necesitan sobre todo para los niños y para los médicos que trabajan todos los días en radioterapia

alemania gracias a amancio ahora lo podrán hacer aquí en españa y en este caso también en el país vasco gracias a él españa estará en la vanguardia

al de la radioterapia gracias a amancio todos los españoles vamos a poder disfrutar de este avance de este tratamiento contra el cáncer con el que no podríamos ni tan siquiera soñar si no es por su donación

oskar matute de eh bildu decía en el congreso de los diputados que inditex en dos mil diecinueve ganó diez mil cuatrocientos millónes de euros y que tributó cero

falso inditex pagó trescientos setenta y dos millónes de euros a la agencia tributaria en concepto de impuestos de sociedades sobre beneficios

oficiales como el informe de auditoría publicado en la comisión nacional del mercado de valores y no base sus informaciones en fuentes afines a su perfil ideológico en este caso un informe del sindicato ela creo que ela no es el paradigma económico en el que bucear para poder obtener información veraz verdad señorías

lo calificó de evasor fiscal es decir de cometer un delito ya que la evasión fiscal o de impuestos conocido como fraude fiscal es una conducta ilícita señores de podemos ustedes que además están y forman parte del gobierno de españa deberían denunciar este hecho en los juzgados pero no nos consta que lo hayan hecho verdad desde aquí invitamos a amancio ortega a que inicie una querella contra los líderes de podemos por calumnias y por acusarle públicamente de un delito que no ha acometido

no soportan que nadie decida libremente dónde donar parte de sus ganancias de sus ahorros sin que ustedes decidan dónde cuándo cómo y por qué han estatalizado

diciendo que tiene beneficios fiscales algo que es falso e insostenible si se miran los datos del ministerio de hacienda

algo que nos beneficia a todos los españoles eskerrik asko martínez andrea

gracias presidenta decía el señor rico

no sé si algo si algo sí sí si la veo sí por eso la he presentado no no sé gracias gracias si algo nos beneficia pues lo tenemos que reconocer no se puede hacer como que no ha pasado nada sí ha pasado

se ha fortalecido nuestro plan oncológico dos mil dieciocho dos mil veintitrés de una manera histórica lo vuelvo a repetir

que yo venga al parlamento y dé las gracias o quiera que el parlamento dé las gracias en función de ese éxito de ese avance que hemos tenido todos en este país

lo voy a conseguir porque vamos a dar las gracias mayoritariamente en este parlamento a la fundación de amancio ortega es normal que los grupos que apoyan al gobierno

lo vamos a conseguir el señor orbegozo también me ha dicho que se sorprendió de la iniciativa

sorprendido todos los años porque estaremos recibiendo buenas noticias y estaremos fortaleciendo no sé si nuestro sistema de salud o nuestro sistema educativo

fortaleciendo con iniciativas sobre esta yo también

el plan oncológico de euskadi dos mil dieciocho dos mil veintitrés es lo que gana con esta iniciativa con esta donación

se instala perfectamente en todas y cada una de las líneas de este plan y lo fortalece el señor hernández bueno vamos a ver la fundación amancio ortega es uno de los pilares privados

y por su vinculación no solamente en el ámbito sanitario en el ámbito social de una manera impresionante y usted lo sabrá seguramente y además la mejor política social dentro de lo que es el grupo inditex es crear empleo

inditex practica la mejor política social que hay en una

crear empleo y eso lo hace bien y eso lo hace bien y eso nos beneficia también a todos miles y miles decenas de miles de puestos de trabajo bueno pues eso nos beneficia

las experiencias empresariales privadas de éxito para usted

en su discurso además es totalmente catastrofista es como

y además no se compadece con un avance que supone

acusaciones falsas no seré yo quien desvíe la atención desde luego entrando en el juego que usted

esa cantidad de cosas digo pero qué está haciendo en este momento sentado en el parlamento el señor hernández y no está en el juzgado en la audiencia nacional en el juzgado de instrucción o en cualquier juzgado

no sé qué porque con ese discurso catastrofista y además y además pero sí está pactado con el gobierno de españa

saber quién está en el gobierno de españa está usted señor hernández está usted en el gobierno de españa

ahí no han dicho nada no han dicho nada no han puesto elevado el tono no han recibido el acuerdo no les he oído decir nada

también está usted en el gobierno de valencia y

ha recibido esta donación desde luego con los brazos abiertos hombre yo creo que estas incoherencias de qué nos habla señor hernández es decir saca el discurso otra vez del comunismo del capitalismo todo lo que son

de lo que usted son las esencias ideológicas pero la sociedad hoy no funciona así desde luego nosotros hemos hecho un planteamiento que casa con la realidad con las necesidades y que las buenas formas es decir en ese sentido pues las enmiendas de totalidad que han presentado pues bueno pues tienen elementos

de este debate pero sí me ha hecho gracia la enmienda de totalidad de la señora

a todos ustedes también constantemente madrid la que más empleo la que más crecimiento económico tiene la que avanza en todos los ámbitos permanentemente bueno la obsesión en madrid pues bueno pues sigan ustedes acabo ahora mismo

crear un protocolo para donaciones vamos a ver ya existe ya está el protocolo una necesidad

existen los dos y ya tenemos el protocolo ese es el protocolo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

no sé si es compatible desde luego yo no voy a eludir que estamos en el gobierno de españa y jamás he eludido que participar en un gobierno tiene sus contradicciones porque al final un gobierno de coalición como el de españa es producto de una correlación de fuerzas internas

estando ya en el gobierno de españa y así lo ha hecho unidas podemos usted mismo y algunos otros portavoces han citado aquí algunas compañeras y compañeros de unidas podemos

siendo ya nuestra coalición parte del gobierno de españa porque se nos dice ustedes desvían el debate y nos dicen no el debate cuál es el debate qué es lo que nos proponía el señor barrio

pues efectivamente yo no eludo ningún debate yo he dicho las razones por las que mi grupo cree que un parlamento

y las razones tienen que ver con varias cuestiones

porque no estamos de acuerdo con el tipo de donaciones finalistas lo hemos dicho más de una vez sobre todo porque en este caso porque se propone un agradecimiento a una persona concreta sabemos y hemos explicado nuestros argumentos que detrás de esas operaciones

de este empresario y por lo tanto no eludimos el debate ni desviamos la atención décimos las razones por las que no estamos de acuerdo con que un parlamento le dé las gracias

yo no hago ninguna acusación sin fundamento y en mi intervención he hablado de sentencias y de acuerdos de la empresa

por hechos demostrados de explotación laboral extrema y por lo tanto nosotros pensamos que alguien que dirige compañías con estos comportamientos nada que agradecerle porque en un momento concreto haga determinada donación y además no podemos eludir que detrás del debate concreto del agradecimiento se esconde un modelo político

detrás del agradecimiento concreto que nos propone hoy el señor barrio se esconde

político concreto que es el modelo del partido popular continuamente diciendo bájense los impuestos la izquierda quiere subir los impuestos

los servicios públicos con las donaciones de amancio ortega y de toda esta buena gente les sobra el dinero

con eso y así lo décimos y nos preguntan dicen y qué harían ustedes si estuvieran en el gobierno vasco

respondido a sí mismos estamos en el gobierno de españa con la correlación de fuerza que tenemos nos ha rechazado se ha firmado pero luego nos dicen no desvíen el debate el debate es

no debe dar las gracias por este tipo de donaciones porque un agradecimiento a través de una proposición no de ley o de una moción implica cuestiones políticas en nuestra opinión de primer orden y nosotros no podemos compartir que esto se haga y la crítica al tipo

máquinas estaban dentro de las necesidades ya identificadas en el sistema sanitario pero en el sistema sanitario compartirá usted conmigo que hay otras necesidades igualmente identificadas

quién ha decidido que sea a estas concretas

la sanidad pública en el caso de euskadi la consejera en el caso de españa la ministra no amancio

y le tenemos que dar las gracias por supuesto porque nos ha dado unos durillos

en el capital económico de este señor una parte importante del cual ganado de forma desde luego para nosotros muy injusta por lo tanto sí nosotros vamos a rechazar que se le dé las gracias de manera pública desde un parlamento

y no eludimos ningún debate damos las razones son
nuestras razones para decir que no le damos las gracias a amancio ortega eskerrik asko hernández jauna

en escasos diez segundos echar atrás la propuesta de eh bildu pero la realidad es que

y su modelo es este donde un rico no paga impuestos o paga menos impuestos porque es el modelo que ustedes están auspiciado

y cuando llega el momento de la donación se le hace un homenaje

y los servicios públicos los servicios públicos se pagan con impuestos públicos y no se puede hacer este tipo de gracietas sinceramente me parece una falta de respeto hacia la sanidad pública sí

el que ustedes pretendan que este parlamento haga aquí una loa y una no sé una loa a una persona concreta cosa que me parece

miles de donaciones de personas anónimas que hacen donaciones cada uno con lo que puede pero no significa eso que haya una campaña que se le da gratis a esa persona porque detrás de esto hay una campaña publicitaria a las empresas de esta persona y eso lo sabe cualquiera fotos y demás en esta ocasión

y dijimos que aquello no procedía probablemente ahora se ha tomado ejemplo porque de verdad de verdad tenemos que hacernos una foto con un donante hombre por favor donaciones existen y van a existir siempre pero eso no quita

las donaciones podrán ser no finalistas porque no creo
los gastos públicos los tenga que decidir un señor desde galicia eskerrik asko pinedo andrea euskal sozialistak rico jauna

gracias señora presidenta empiezo diciendo lo mismo que he

no veo la necesidad de la iniciativa una vez que un grupo la trae nosotros nunca nos vamos a plantear si lo ha pensado bien o no

cuota de iniciativas y entramos al debate pero dicho esto señor barrio les ha tachado de incoherentes

usted que ha venido aquí a defender el estado de la nación representa a un partido el partido popular

los recursos públicos para comprar estas máquinas porque si han leído el convenio así es

que no van a apoyar esta iniciativa van a apoyar los presupuestos generales del estado que van a comprar estas máquinas esto es la magia de la política ahora que se acercan

pero hombre también demuestra yo creo que hay determinados debates me ratifico que nos hacen perder casi una hora de tiempo

un acuerdo de la pasada legislatura que no ha variado mucho teníamos posiciones que tampoco han variado demasiado con una diferencia que quien hoy quiere venir aquí a este atril a defender esta donación y poner en valor lo que significa

de esos recursos públicos y quienes no quieren ratificar esa donación aquí públicamente van a hacer con su voto

adelante y yo creo que este tipo de cuestiones se las tenemos que ahorrar a la ciudadanía yo creo que no son nada yo creo que no son nada edificantes que no nos provocan absolutamente nada y también por eso mi grupo no ha llegado a una transaccional con el grupo proponente porque no compartimos que el debate de hoy fuera el modelo y se lo vuelvo

en el modelo ustedes elkarrekin podemos el partido nacionalista vasco y nosotros

estaríamos bastante de acuerdo y tampoco señor hernández la cuestión es un tema de debate de fiscalidad porque además no me voy a extender pero hemos ofrecido una

añadir un punto a nuestra enmienda en el que se habla precisamente de ese fortalecimiento sistema fiscal progresivo equitativo etcétera etcétera en el que tenemos absolutas coincidencias yo creo que aquí se ha venido hoy con una serie de prejuicios

nada a la ciudadanía lo cierto es que con esta donación la ciudadanía vasca en este caso va a contar con una máquina de protonterapia y eso es bueno pero es bueno señor hernández y eso sí se lo reconozco porque existe una apuesta decidida e indubitada por el sistema público de salud

jamás podemos permitir que nuestros sistemas de salud dependan del altruismo se lo he dicho estas máquinas que van a venir

ha puesto el dinero encima de la mesa pero se incluyen dentro de un plan que contempla más de setecientos millónes de euros eso usted lo sabe porque pertenece al mismo gobierno que mi partido

ni al gobierno de españa ni al gobierno vasco en qué tiene que gastar esos recursos públicos hay cuestiones que han sido perfectamente prefijadas por gobiernos que creen de forma indubitada en ese mantenimiento de los servicios públicos de la titularidad pública del servicio de salud porque es uno de nuestros grandes tesoros en este sentido yo

nuestra enmienda aquí no se trata de beatificar a nadie aquí no se trata tampoco de

que es importante pero nuestro objetivo sigue siendo el de reforzar el carácter público de nuestra sanidad y eso es lo que se recoge en nuestra enmienda nada más y gracias

jarraipena emateko ezta y una cosa es hacer crítica como ha dicho usted que usted bueno la formación a la que pertenece está integrada

y otra es exigir a los demás lo que uno no hace ese es problema y por eso le preguntaba yo expresamente que a ver usted que haría en esta situación porque

el gobierno de españa y además es una donación muy especial que luego se hace una cesión a las comunidades autónomas etcétera es un tema

etcétera pero es que aquí no tenemos ese modelo es que aquí no existe ese modelo entonces por eso en una situación tenemos un modelo propio de fiscalidad

los servicios públicos si un gobierno autonómico si el lehendakari tiene que aceptar o no esa donación yo creo que

el problema es que luego se utilice eso para hacer crítica política en euskadi ese es el problema que es lo que la gente no entiende o sea lo que la gente no entiende es que

pero que luego para criticar al gobierno vasco se utilicen una serie de argumentos hablando de la fiscalidad de los yates

con la realidad de aquí y por eso es por lo que me interesaba

al respecto beraz rico jaunak

gracias señora presidenta señor rico por mucho que lo diga a veces la magia

es un acuerdo en el que llegan diferentes grupos políticos con una letra pequeña que es la que usted no ha dicho pero le puedo prometer que no es magia dicha esto acabaré mi intervención como he empezado con un refrán

en el suyo el refranero español es maravilloso da para mucho señores de podemos

la evasión fiscal creo que lo desconocen y yo he hecho un pequeño extracto de situaciones diferentes que me han dado una gran luz en cuanto a este tema son tres ejemplos muy claros que se les voy a explicar y verá cómo me da la razón

lo que hace echenique esquivar las notificaciones de hacienda y hacer una complementaria cuando te pillan

informar que las obras de la sede cuestan menos para eludir pagar los impuestos al ayuntamiento

señores de podemos para ser ustedes tan críticos con la evasión fiscal llama la atención que la utilicen tanto eskerrik asko martínez andrea

la autoridad independiente de responsabilidad fiscal constata el fuerte esfuerzo inversor en la alta velocidad

afirmar que si estamos debatiendo esto aquí como ha dicho el señor fernandez de betoño es gracias

estos largos meses presentando distintas iniciativas y mociones en los distintos ayuntamientos de bizkaia y de cantabria y también en las juntas generales de bizkaia y

hablado entre los distintos grupos para poder registrar esta iniciativa es verdad que las prisas de otros grupos en el congreso nos hicieron también

aquí a tiempo en el parlamento ayer se produjo el debate en el congreso que nosotros respaldamos la iniciativa

con el último punto que es el que se sale del consenso que tenemos

santander pero bueno esperemos que en el día de hoy se apruebe

del parlamento vasco para que las inversiones que algunas ya empezaron

van a desarrollar durante los siguientes años se hagan cuanto antes porque la urgencia cada día es más grande la plataforma se constituyó para reivindicar un servicio digno del servicio del tren entre santander y bilbao y especialmente en los valles que les afectan especialmente

afecta un servicio que se había reducido de una forma brutal a un servicio al día

de volver no tenía ningún tipo de sentido y bueno pues ahora se ha recuperado la frecuencia anterior ya ha sido todo explicado voy a intentar resumirlo se recuperaba tres

en los dos sentidos una mejora que se llevaba meses reclamando bueno

ha vuelto a los servicios anteriores al inicio de la pandemia pero a todas luces es un tema

no miramos las cifras de usuarios actuales porque están trampeadas por la ausencia de servicios un servicio además que como decía tenía una frecuencia totalmente insuficiente pero además es una línea anticuada

superior al que se tenía incluso a principios del siglo veinte en el conjunto de la línea ya ha dado también el señor fernandez de betoño los datos de lo que tarda ahora

y entre bilbao y santander que en los últimos años también se ha ido ampliando hacia

las tres horas cuando yo mismo personalmente hace doce años lo hice en dos horas y media que tampoco es que fuera una cifra muy competitiva pero

bere herrietara y es verdad y coincido también con lo que ha dicho el señor fernandez de betoño que esto han sido decisiones políticas durante décadas que en el estado español se han priorizado

de alta velocidad dejando de lado totalmente y utilizando ese nombre que tienen que quizás no sea el mejor como secundarias a las líneas que unen y que vertebran el territorio el deterioro de los servicios de media y larga distancia

desde los años ochenta una decisión política de los dos grandes partidos y apoyados también por el partido nacionalista vasco durante décadas de

a la alta velocidad si ven las cifras de inversión en alta velocidad y en vías convencionales en el estado español son absolutamente escandalosas más de un noventa por ciento en la alta velocidad

las cifras en veinticinco años se han invertido cincuenta y dos mil millónes de euros en la alta velocidad escasamente determinada además también aquí en euskadi lo que supondría

euros frente a la inversión que se hace en cercanías que es absolutamente

que estamos viendo que es absolutamente demencial igual que ahora en vez de seis horas veinte que se tardaba antes de la pandemia para ir de bilbao a barcelona se tarde siete horas y lo mismo con la línea madrid que en vez de cuatro horas y media desde bilbao se tarde más de cinco

por tanto toca a revertir esta situación es positivo que tengamos un acuerdo amplio en la defensa de esta línea

que primero es más baratos segundo costaría menos tiempo también realizarla y seguramente lo conseguiríamos mucho antes y podría vertebrar

y no solo las capitales es positivo que tengamos este acuerdo para impulsar las inversiones en la línea

santander actualmente existente de renfe feve en tres sentidos instando a las administraciones actuales que son los gestores de la línea para que

sin tener noticias también de los planes del gobierno vasco en el momento en el que se haga la transferencia de cercanías eta baita ere oraingo

detalles de los trabajos que estamos de acuerdo con lo que se aprobó esperemos que esto se lleve adelante cuanto antes porque no pueden esperar la gente que vive en los ciudadanos y ciudadanas de carranza de bizkaia y de cantabria no pueden esperar

las inversiones pendientes en esta línea eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

hoy se viene a hablar aquí de la línea bilbao santander con ciento veinticinco años de antigüedad que comunica bilbao con santander en un tiempo de tres horas hombre

y ya meses acumulando retrasos en el servicio

escasez de horarios y problemas de seguridad accesibilidad en estaciones electrificación

todo esto se ha dicho ya aquí en las anteriores intervenciones se ha acusado al partido popular de no tener en cuenta esta línea

ana pastor incluyó en la ruta del gobierno en materia de infraestructuras en dos mil doce el proyecto dos mil doce dos mil veinticuatro por el cual se dotaba económicamente con quinientos treinta millónes esta línea para modernizarla y

vecinos desde cantabria santander hasta bilbao sin embargo este plan lo tumbó el señor ábalos y lo dejó para un nuevo plan para más adelante para más el futuro

ha habido restricciones y ha habido y ahora recuperamos los tres

que hace esta línea pero claro qué pasa que los perjudicados son los vecinos entonces ayer

de estas me he quedado en blanco de esta línea perdón gracias

de algunos tramos porque son necesarios

y se ha visto por lo tanto esto no quita que se lleve el mantenimiento y que se lleve a cabo la información la planificación de un proyecto que ya presentó este partido

en el año dos mil tres para qué para hacer una conexión entre bilbao y santander pasando por castro esto era una demanda de los vizcaínos y esto es lo que se recoge

a su propuesta era simplemente para entrar a negociar porque en tanto en cuanto no se solucione la problemática de los vecinos de encartaciones para viajar para transportarse a bilbao es necesario que la diputación implemente los servicios de transporte

aquellos municipios que no tengan acceso a una línea de autobús para llegar a lo que es

y para en realidad darles un servicio necesario que tanto necesitan valga la redundancia lo que está claro es que es interesante que podamos llegar a un acuerdo y que entendamos que lo que prima lo que prima en estos momentos son las necesidades de encartaciones que no pueden seguir sufriendo la decadencia de una línea que no les da el servicio adecuado el servicio que se merece la población

sobre la línea ferroviaria santander bilbao que traen a esta cámara los grupos parlamentarios eh bildu y elkarrekin podemos izquierda unida y podría haber sido una iniciativa

si hubiéramos tenido la oportunidad pero porque es una iniciativa que también se firmó de forma conjunta en bizkaia en juntas de bizkaia junto a nacionalistas vascos pero bueno no han querido y

afeándoles la conducta a los miembros de eh bildu y elkarrekin podemos izquierda unida que traen esta iniciativa también acepto las disculpas del señor

comienzo con los antecedentes de este asunto y es que el ferrocarril santander bilbao junto con el de balmaseda bilbao son las únicas líneas de ancho métrico

al estado en la comunidad autónoma del país vasco realmente es una y griega con un tronco común desde bilbao hasta aranguren y en esta se divide en dos ramales un ramal hacia santander bilbao santander y otro ramal hacia león bilbao la robla

electrificado en todo su territorio vasco tramo bilbao karrantza no estando electrificado un tramo en territorio cántabro concretamente orejo karrantza

tienen que ser operados por locomotoras mixtas diesel eléctricas ha sido y es una línea en constante decadencia y desuso

y afectando de manera singular en la comunidad autónoma del país vasco al valle de karrantza

diecinueve y lo que hemos vivido es que la movilidad es un elemento fundamental para el desarrollo de la vida de la ciudadanía también hemos visto que fruto de la covid diecinueve se han realizado una serie de actuaciones sobre los medios de transporte colectivos algunos de ellos reduciendo frecuencias como es el caso de esta línea

durante la pandemia los servicios regulares se limitaron a uno o dos servicios por día y sentido habiéndose recuperado los habituales cuatro servicios por día y sentido en días laborales

en un debate como se ha señalado aquí en el congreso de los diputados los grupos que sustentan al gobierno así lo pidieron a la ministra de transportes movilidad

hay que destacar que el trayecto balmaseda bilbao tenía una duración

también se solicitó en ese debate que el servicio sea más rápido y de hecho

adjudicó un estudio informativo para establecer una línea bilbao santander en cuarenta minutos los socialistas estamos comprometidos también con el transporte accesible sostenible y de calidad que paulatinamente sustituye al transporte privado y para ello sabemos que hay que estar en constante y permanente mejora revisión e inversión en los transportes que hacen esto posible

la comarca de enkarterri para acercarse a bilbao una opción que es más sostenible que es más respetuosa con el medio ambiente y que debía ser una opción utilizable por los ciudadanos de la comarca

los que la han utilizado saben los inconvenientes con los que cuenta la línea que son muchos y esto relega a este medio como una de las opciones óptimas a la hora de elegirla en concreto ya se ha dicho aquí escasas frecuencias infraestructuras que no se encuentran en buenas condiciones de mantenimiento y

parece que la mayoría de los grupos coincidimos en lo que en el diagnóstico y desde luego en lo que tenemos que ir haciendo poco a poco para recuperar esas frecuencias y que sea más rápido

trenes y la electrificación del tramo orejo karrantza nos van a encontrar a los socialistas vascos

con un plan integral con medidas urgentes en favor de un transporte público social y de calidad sobre cuáles también son los servicios que tenemos que garantizar y cómo garantizarlos y sobre todo

el foco en las políticas que mejoren la vida de los ciudadanos de la gran mayoría de los ciudadanos que todos los ciudadanos de nuestro país se sientan igual tratados que tengan las mismas condiciones y las mismas oportunidades por todo ello hay que instar a las administraciones competentes para que mejoren

las negociaciones para alcanzar las transferencias en materia ferroviaria cuanto antes y adoptar medidas tanto en las infraestructuras como el servicio

como he dicho al inicio esta hubiera sido una iniciativa que mi grupo parlamentario socialistas vascos hubiera presentado y suscrito en todos sus términos

promovido pero votaremos a favor nada más muchas gracias

el partido nacionalista vasco ha conseguido un acuerdo al respecto para los presupuestos generales del estado hemos conseguido que se acepten dos enmiendas a dichos presupuestos

el nivel de servicios para el primer trimestre del dos mil veintidós en aras a aumentar la frecuencia de la línea y además

el tramo entre aranguren y karrantza horretaz aparte

el grupo vasco logra el apoyo del congreso para mejorar la línea ferroviaria santander bilbao iniciativa del partido nacionalista vasco en madrid instando al gobierno español a continuar con las mejoras en la línea ferroviaria de santander bilbao

hemos logrado incorporar dos enmiendas a los presupuestos generales del estado asteartean bertan

este mismo martes se ha aprobado en el congreso una iniciativa por parte del partido nacionalista vasco para mejorar

el movimiento se demuestra andando y acabo de demostrar

en este caso sigue trabajando y consiguiendo acuerdos para la mejora de esta línea bilbao santander no sé si el resto

bastante bien lo que pasó está en las actas también del debate de juntas generales de bizkaia

lo que pasó no te entiendo con la mascarilla no

y lo que pasó en el congreso lo que pasó en el congreso es que estábamos varios grupos incluido el partido nacionalista el grupo del partido nacionalista vasco en el congreso del grupo vasco porque hay más diputados y diputadas vascas en el congreso

me dicen por distintos lados entonces ahí se estaba negociando se estaba negociando una iniciativa conjunta en un tema que en lo relativo a la línea bilbao santander que es lo que nos preocupa a todos y a todas creo que estamos de acuerdo y hubo una

concreto que es legítimo para registrar una pnl que es la que se aprobó ayer sin nuestra firma pero con nuestro apoyo porque no estábamos de acuerdo con el último punto porque

y no estamos hablando de otra infraestructura que es la línea bilbao santander

pero que no tiene por qué ser y vuelvo a decir y nuestra postura en este momento es que no tiene por qué

de altas prestaciones que una bilbao santander con otro tipo de precio en lo que es la ejecución de la obra y que vertebre muchísimo más el territorio y ante esa situación en el congreso de los diputados pues sí oye alerta vamos a traer el debate al parlamento

y lo único que y le pido disculpas en ese sentido de nuevo a la señora san josé que

ha mostrado voluntad de acordar esta iniciativa pero

de traer un debate y un consenso que se había alcanzado en las juntas generales al parlamento vasco en ese sentido y en esa parte en esa parte no me arrepiento en absoluto de haber traído ese debate al pleno del parlamento

al partido popular si no hemos aceptado la enmienda por lo menos por nuestra parte es porque autobús ya hay y servicio de taxi ya hay por desgracia

en condiciones y todas las medidas paliativas que tenga que poner la diputación

gran parte de lo que no debería de asumir porque no tiene la competencia en transporte pues también

que se puedan poner isiltasuna mesedez que se pueden seguir financiando y poniendo en marcha pero que no son el objeto del debate que es
la línea y me quedo para acabar con este consenso que espero que más que animar sea casi de exigencia para que las obras que están aprobadas

o que se aprobará de los presupuestos generales del estado pues se ejecute

ya los vecinos y vecinas de carranza llevan demasiados años esperando las mejoras en esta línea eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

bilbao santander lo que quiero decir es que mientras que se haga ese mantenimiento habrá que dotar a los vecinos de un servicio adecuado en ese sentido

quiero decir que a la propuesta que nosotros hicimos con respecto a mejorar o a crear una línea de alta velocidad

es atendiendo a las necesidades de los vecinos vizcaínos esto no quiere decir que tengamos que dejar y perder infraestructuras que ya están y que tendrían que haber tenido un mantenimiento adecuado por lo tanto nosotros

en la iniciativa presentada sabiendo que tiene que existir un mantenimiento pero también tenemos que atender todas las necesidades de los vecinos y entre ellas está la línea bilbao santander pasando

de lo que se ha hecho aquí y lo que se ha hecho aquí ha sido traer una iniciativa que se había acordado por todos los grupos en juntas de bizkaia y ustedes la han traído solos

pero hay que centrar el debate o sea aquí no estamos hablando de lo que se ha hecho en madrid en juntas de lo que se ha hecho en cualquier sitio el debate es la mejora de las infraestructuras y servicios y es verdad que es manifiestamente mejorable

como ustedes saben perfectamente esta es una competencia del ministerio de transportes movilidad

y a la señora larrea decirle que desde el año dos mil once

repito desde el año dos mil once y con respecto a su enmienda efectivamente como ha señalado el señor martínez estamos hablando de línea ferroviaria no de autobuses yo

en base a ellas pero los recursos desde luego no son ilimitados y siempre hay más necesidades que recursos pero desde luego creo que está clara la voluntad del gobierno de españa de impulsar esa movilidad sostenible fomentar los servicios ferroviarios y en particular los servicios públicos y el transporte de proximidad
y creo que vamos por muy buen camino muchas gracias eskerrik asko san josé andrea

komentatzeko baina bueno en este caso estoy de acuerdo con el señor betoño en su enmienda comentaba el poner en marcha una línea de autobús y en su defensa ni siquiera ha mencionado la palabra autobús yo creo que su enmienda es dónde vas manzanas traigo porque el problema no se soluciona poniendo en marcha una línea de autobús si es que bizkaibus ya tiene líneas a carranza líneas pues bueno considerablemente buenas

sabemos también que los caminos y las carreteras de acceso a ese municipio pues tienen muchas dificultades y teniendo eso en cuenta también

carretera en distintos tramos con lo cual ya veis que donde tenemos competencias actuamos pero insisto es que el problema no es ese

existe una dejadez absoluta por parte de adif y por parte de rene

está trabajando más allá de declaraciones y de firmas de acuerdos en instituciones vascas sin que después se trasladen a donde se tienen que trasladar que es